no sé si habréis visto la película la selva esmeralda y

cuenta la historia de un ingeniero estadounidense que trabaja en la construcción de una presa en el amazonas

civilización y la selva y su hijo desaparece su hijo de siete años

de estas que ahora se dicen no contactadas durante años en sus vacaciones

a su hijo y al de diez quince años le encuentra ya es un chico mayor completamente integrado en esa tribu

entonces se vuelve a donde el jefe y le dice tú eres el jefe dile que venga conmigo

si dijera a las personas libres que hagan lo que tienen que hacer dejaría de ser el jefe ese creo que debe ser el concepto del poder que debemos ejercitar

sirve en algunos casos para determinar quién puede estar al mando pero un poder desprovisto de todo concepto de autoritarismo hau da guk bultzatu nahi duguna

en otra de estas batallitas que le he prometido al señor uria que iba a contar

la atención se venga un poco arriba el almirante ateniense temístocles le dijo al almirante espartano euribíades que debían atacar a los persas y euribíades que estaba al mando se negaba se cabreó

y temístocles le dijo pega pero escucha pega pero escucha

y aquí vuelvo a repetir el gobierno vasco tiene la capacidad ejecutiva porque tiene el mandato democrático para ello

asociativo todo un mundo en el sector del comercio que tiene mucho que decir que tiene que ser escuchado y no solo escuchado sino que tiene que ser copartícipe en la toma

afortunadamente hoy entre muchos análisis y en la mayoría de los casos ya eran conocidos por todas las personas conocedoras del sector del comercio vamos a adoptar una serie de resoluciones concretas entre ellas una muy importante referida al modelo de gobernanza en el sector y me refiero a la reactivación de la

comisión consultiva del comercio una comisión

con los votos necesarios en la negociación que hemos hecho entre los grupos incluidos el de los partidos que apoyan al gobierno cuya reactivación decía va a ser un instrumento necesario para que precisamente esa gobernanza compartida en la que el gobierno tiene el papel ejecutivo pero que todos los demás

palabra y protagonismo pueda tener un marco pueda tener un punto de encuentro

eficiente y democrático un liderazgo compartido y a partir del día de hoy tenemos el compromiso de la reactivación de esta comisión consultiva renovada para su representatividad y para crear órganos de trabajo que puedan hacerla también más eficiente esan dut goizeko saioan hitz egingo nuela

una y otra vez en este pleno y fuera de este pleno hasta que llegue el momento en que este proyecto nefasto e inaceptable quede definitivamente paralizado

no nos vamos a cansar una y otra vez hasta que ese posicionamiento que todos sabemos que es mayoritario en contra de este proyecto

y sobre todo en actuaciones concretas que lleven a demostrar al señor alcalde de hondarribia que está solo en esto si es que realmente está solo en esto y que por tanto

a que abandone este proyecto este proyecto que con la voluntad expresa de saltarse no la legalidad sino la voluntad también democrática de esta cámara

que estaba referida específicamente a la paralización de proyectos de este tipo

de forma exprés en hondarribia es como decía un desafío a la voluntad democrática de esta cámara y es una amenaza inminente y gravísima a la pervivencia del pequeño comercio en la zona de bidasoa y sabemos

porque este tipo de macrocentros han producido ya esos efectos en otras zonas donde se han instalado hoy tenemos la posibilidad también no quiero adelantar acontecimientos pero parece que hay acuerdo suficiente para ello de aprobar una resolución que solicite al gobierno

al actual y a los futuros encargados de la redacción de los presupuestos

los presupuestos destinados al área de comercio

a razón de un veinticinco por ciento de incremento anual

victoria pírrica que se refiere a aquella victoria que es casi una derrota pero yo en este caso le diría señora consejera o señores representantes de los partidos que están

el rango de ley es simplemente la expresión de la voluntad política a este parlamento

que es indefendible e insostenible la discriminación presupuestaria de un sector de la dimensión económica y social como la que tiene el comercio y es que llega el momento que algunas cosas que damos por aceptables

son inaceptables y pasa el tiempo y pensamos como cuando había ceniceros en los trenes o se podía fumar delante de la gente con total naturalidad nadie le daba excesiva importancia el que era educado pues le decía señora le importa que encienda el puro delante suyo y tal eso el que era educado verdad se fumaba con total naturalidad y hoy nos parecería una barbaridad

una barbaridad que un sector de la dimensión del comercio tuviera una marginación presupuestaria de este calibre y que con apenas diecisiete millónes de euros se pretendiera hacer

de un sector enorme con una profunda proyección social

por eso les digo que aunque hoy en términos parlamentarios pueda ser una derrota si es que efectivamente se materializan esas voluntades en votos mayoritarios a la larga va a ser el principio de un cambio de un cambio que todos debemos entender como positivo cuando se aprobó precisamente a iniciativa del partido socialista y también con el respaldo

al gobierno de aquel entonces y hoy esgrime ese incremento de cinco por ciento anual

que sea así también en el ámbito del comercio y que dentro de unos años

salto hacia adelante en los presupuestos porque detrás de ese salto adelante en los presupuestos tiene que venir algo que es mucho más importante que es un salto adelante en las políticas

que no es precisamente una afición que sea motivo de mis simpatías pero que estaba convertida en una especie de museo era un bar que tenía todo tipo de recuerdos carteles

que se puede asociar a la tauromaquia y por una cuestión de cambio de alquiler esa taberna tuvo que cerrar repito

mi afición favorita la de la tauromaquia pero no podemos permitir que tiendas que comercios que establecimientos que llevan décadas abiertas porque estén pasando

por una brusca subida de los precios de alquiler se vayan a pique y menos si esas tiendas aportan además de su propia antigüedad un plus en el sentido arquitectónico por la propia configuración de la tienda o en el sentido mobiliario por la riqueza que puedan

gracias señora presidenta señor lehendakari consejera señorías representantes sectoriales que siguen aquí

presento en nombre del grupo popular las propuestas para contribuir a la competitividad del comercio minorista

hemos expuesto en esta tribuna que están hechas con la mejor voluntad

sino que la voluntad es que sean eficaces para su actividad para la actividad comercial

un análisis previo lo que nosotros entendemos es que el departamento del gobierno vasco en el ánimo de colaborar para la actividad comercial para la mejora de la actividad comercial tiene que colaborar con las demás entidades de la administración y en este caso los ayuntamientos

y poder poner medidas eficaces hay que tener un análisis real

que identifique los espacios de oportunidad para la actividad comercial en las zonas urbanas y esa es una propuesta que hacemos nosotros

un análisis porque eso te va a dar unas pautas para que la experiencia y la medida tenga éxito

con el ocio y los servicios creemos que hay que combinar actividades para generar oportunidades y esa es una cuestión que en algunos sitios

medidas de este tipo para que determinadas zonas vuelvan a recuperar la actividad comercial también junto con los ayuntamientos entendemos que el gobierno

en los municipios para el fomento del comercio local intentando disminuir el número de locales inactivos en los principales centros urbanos comerciales si se dan una vuelta por aquí a menos de doscientos metros se encuentran con media calle en pleno centro de vitoria vallada por completo dieciséis meses vallada no hay un proyecto detrás metros y metros de espacio comercial cerrados y no se sabe francamente esto no se puede permitir y si el ayuntamiento no es capaz de resolver esta cuestión tiene que haber alguna autoridad

no se puede tener en medio de una ciudad como vitoria la capital de euskadi media calle vallada durante dieciséis meses eso ha hecho un efecto

y está generando un perjuicio incalculable para el centro de la capital alavesa para vitoria también creemos que en

para la población en nuestros pueblos de nuestras ciudades destacando y valorando su contribución

qe hay que ayudar a aumentar la capacidad competitiva les decía esta mañana

programas de ayudas para la implantación de la mejora continuada que ofrezca valor añadido tanto a la venta del producto como a la gestión misma del negocio como puede ser

servicios especiales a la clientela y la sostenibilidad hay que valorar también cómo atendemos qué valora hoy el cliente qué valora hoy el consumidor pues entre además del valor del producto valora la atención la buena imagen las buenas practicas el trato de los establecimientos comerciales y de sus trabajadores y con el fin de mejorar estas habilidades creemos que sería bueno

para que demos la imagen que corresponde al comercio una imagen de respeto al cliente pero de trato de favor y de

creemos que hay que colaborar y apoyar con los establecimientos comerciales para la implantación y el mantenimiento de certificados de calidad esto también da valor añadido al comercio y al producto apoyar a las empresas comerciales para la adecuación física de sus establecimientos en prácticas sostenibles como pueden ser medidas de ahorro y la eficiencia energética comercio inteligente

u otras actuaciones que contribuyan a mejorar la sostenibilidad de la actividad comercial nos parece muy relevante hoy el ciudadano se fija muchísimo

una adecuación a la demanda y a las preocupaciones de la sociedad por lo tanto es una manera de empatar con el cliente con el consumidor

esto lo venimos ya aprobando en esta cámara en anteriores ocasiones también es muy importante la formación en este ámbito y nosotros creemos que es preciso revisar el mapa de cursos formativos del propio gobierno vasco

este bien identificado que se identifiquen sus carencias con el objetivo de adecuarlo a las nuevas necesidades concretas del sector

creemos que hay que subvencionar y es así como lo expresamos en nuestras propuestas

al cien por ciento los planes de formación específicos para subsectores del comercio de las asociaciones de comercio local potenciando campañas de sensibilización ante la necesidad de estar formado

y contenido con las necesidades del comerciante todo ello con el objetivo de mejorar

consideramos que es importante impulsar medidas de apoyo y fomento al emprendimiento y propiciar oportunidades de capacitación en excelencia competitividad

emprendedoras creemos que hay que reforzar las medidas rejuvenecimiento del sector facilitando el relevo generacional y la continuidad de los comercios elaborando un registro de negocios

empresarial y ofreciendo intermediación para la incorporación de emprendedores a dichas actividades es verdad que hay un plan

el resultado es bastante pírrico en mayo no tenemos muchos datos hemos pillado algunas noticias pero en mayo desde la cámara de comercio de bizkaia se decía que desde enero de dos mil catorce que se inició este plan solo

la web actualmente ofrece veintiséis establecimientos en oferta en ese registro después de tres años y medio nos parece

en la cámara de comercio de álava nos decían que en este periodo se habían cerrado

tres años y medio se recordaba esta mañana que en este periodo de tiempo

han dejado de existir como autónomos por lo tanto creemos que los datos comparados pobres y por eso nosotros insistimos sabiendo que hay un programa pero es que ese programa probablemente hay que reforzarlo hay que adecuarlo

con los recursos que se ponen encima de la mesa por lo tanto como les decía hay multitud

todos trabajando en esto supuestamente o así lo dice el texto y el resultado es pírrico por lo tanto esto sí que necesita reforzar

estas actuaciones también lo decíamos esta mañana queremos y creemos necesario imprescindible recuperar el observatorio del comercio

dice la señora consejera y así nos han informado que están a punto de lanzarlo pues nos parece bien

nos parece bien que se relance y que contribuya a formar informar y poner al servicio del comercio los datos que le son imprescindibles para hacer una proyección de sus trabajos mucho más adecuada a la realidad también pedimos al gobierno que elabore un informe sobre cómo se deben mejorar las condiciones de aprovisionamiento distribución y oferta en las zonas rurales cómo debe ser el comercio rural

de dinamización se puede satisfacer mire una

lo conozco hace treinta y cinco años puedo decir que en este momento prácticamente no tiene ningún comercio

pocas horas está la farmacia el centro médico

la panadería está a punto de cerrar francamente es tremendo pero es que eso está pasando es que no hablo de pueblos de cien habitantes es que hablo

francamente merece una actuación de urgencia nosotros creemos que hay que hacer un estudio de cómo se puede tratar y qué

combinado con servicios efectivamente todo está inventado hay ejemplos hay modos de cómo actuar y creemos que esto requiere previo estudio un plan de actuación urgente creo que además las personas que peor salen de esta situación son las personas mayores que tienen muchísimas

que están muy desatendidas y con unos recursos muy escasos a su alcance por lo tanto este plan nos preocupa mucho esta medida creo que es muy urgente

se lo tome muy enserio y que hace cuanto antes también insistimos en que el gobierno

a alguna de las estructuras asociativas estar asociado tiene que estar primado si vale lo mismo estar asociado que no estar asociado no va a ver interés y por lo tanto ustedes van a tener un sector disperso individualista

que no le va a poder ser colaborados para aplicar todos los planes medidas

la estructura del sector les ayuda y contribuye que a sus

les conviene tener una estructura asociativa fuerte potente y ágil trabajadora porque son muy trabajadores y hay que felicitarles por los trabajos que hacen y por lo que también nos aportan y nos enseñan a

también que el programa de oficinas técnicas de comercio prime las condiciones previstas hasta el dos mil dieciocho la contratación de técnicos previstos en dicho programa

que se aumenten las ayudas para convenios y estructura a las federaciones agrupaciones y confederaciones acorde con su representatividad

de apoyar la estructura dar contenido a las asociaciones porque en este momento se apoya a la estructura y se vacía de contenido la actividad de las asociaciones y creo que esto no es un bueno modo de trabajar

y en comparación al de otros sectores teniendo su importancia

pedimos un plan de choque en apoyo al asociacionismo por todo eso que le he dicho que es muy importante tener un asociacionismo fuerte

modernización de los comercios es que en los presupuestos que usted tiene para este año señora consejera la modernización de los establecimientos comerciales lo ha reducido en ochocientos cincuenta mil euros ha pasado de dos millónes cien mil a un millón doscientos cincuenta mil euros pero es que este capítulo séptimo

tres millónes cincuenta y siete mil van a los ayuntamientos oiga que lo que hay que modernizar no son los espacios de los ayuntamientos no

hay que modernizar los establecimientos comerciales los ayuntamientos tienen muchísimos más recursos para modernizar los entornos

lo que hoy se ha puesto de manifiesto en esta cámara esta mañana es que necesitamos un plan urgente de modernización y adecuación de los establecimientos

con las demandas del cliente del consumidor en este caso estaba hablando antes de

hay mucho comercio que no es accesible para todo el mundo hay mucho comercio que le faltan servicios propios

hay mucho comercio que requiere de unas inversiones y no estamos a la altura de las circunstancias en este caso señorías

son reales y que junto con el resto de las administraciones tienen que poner en marcha o ayudar a poner en marcha nuevos negocios que contemplen medidas adicionales nuevas medidas que contemplen ayudas para los autónomos para los nuevos negocios autónomos

hay licencias que cuestan años porque la lonja resulta que

alguna experiencia que he conocido yo han tenido

nosotros también entendemos que junto con las diputaciones forales se deben establecer programas de avales financieros específicos para el comercio

también un plan fiscal que evite situaciones de impago del iva mediante el control de las entregas finales de venta online

también instamos al gobierno a transmitir a sus homólogos de la agencia tributaria española la necesidad de aumentar los controles en aduanas y correos esto son circunstancias que se están dando que nos preocupan que preocupan al sector comercial y que creo que si pueden hacer algo sería

bien recibido por el sector del comercio la implantación telemática del control telemático de las facturas esto preocupa muchísimo al comercio minorista muchísimo

formatos con más trabajadores atendiendo a sus mayores capacidades informáticas a fin de facilitar que el público se acostumbre a las mismas y facilitar su inclusión en el sector minorista creemos que debe ser

de regular y que debe estar bien controlado pero que creo que hace falta capacidad de adaptación no toda la población tiene la misma capacidad de adaptación a esto

de mayor a menor para que no genere conflictos que va a ser en el mostrador

y al propio consumidor propiciar un acuerdo con eudel para la busca de una mejora de los controles en la venta ambulante esto también

nosotros creemos que es bueno que se reforme la ley de la actividad comercial con el objetivo de que se las ventas ocasionales en espacios dígase hoteles dígase

porque al final hacen una competencia desleal al entorno pagan muchísimos menos impuestos les sale mucho más rentable y claro pues si yo cojo una semana especial

casi mínimo no creemos que es bueno que se elabore una campaña de imagen del sector minorista con carácter continuado y que estas campañas se hagan

bueno pues una situación que yo creo que ha generado controversia en algunos ámbitos del sector comercial porque se han visto ofendidos por ese que han puesto en la campaña y por lo tanto creo que lo bueno es que se haga de acuerdo con el sector luego la representación de la representatividad y del sector comercial en los distintos entes consultivos

algo que decir y ahí hemos puesto unas cuantas iniciativas que bueno pues las hemos transado con otros grupos para que se

con las participaciones empresariales o en consonancia con la importancia del sector también la composición de la mesa consultiva del comercio de manera que se potencie la inclusión

y ya que estamos hablando de entes colaboradores hombre las cámaras de comercio

porque esta mañana les he anunciado la baja representación que tienen con lo cual difícilmente pueden tener una sensibilidad bien representada en esos plenos y en esas juntas directivas

nosotros también pues lo que le decíamos que le programa de movilización de equipamientos comerciales nos parece muy importante y además debe mejoras

excesivo por lo tanto señora consejera estas son algunas de las propuestas que hemos presentado hemos llegado yo creo que a un acuerdo razonable con el grupo del gobierno y con el resto de grupos y lo que esperamos es que

eskerrik asko mahaiburu andrea si me deja la voz

hemos presentado treinta y uno resoluciones que para nuestro grupo parlamentario han estado centradas tanto en proponer medidas fiscales y administrativas para el pequeño comercio sobre todo para que se pueda hacer frente a la competencia desleal de las grandes superficies

y en este sentido hemos presentado varias resoluciones en torno a la creación de un impuesto medioambiental nosotras desde la convicción entendemos el comercio local el de los barrios el de nuestros pueblos el de las ciudades el que genera sociedad el que genera comunidad y en estos tiempos en los que el neoliberalismo va contra todo lo colectivo

las políticas públicas dirigidas al sector del comercio también se encuentran atravesadas por esta perspectiva neoliberal vamos a poner un ejemplo

donde tiene un comercio local que agoniza y donde se pagan de gastos fijos como media

como esta y más aún cuando ante esta realidad tenemos un corte inglés de diez plantas un mercadona un eroski de gran superficie

y aun así se quiere abrir más centros comerciales y que no se nos malinterprete

pero sí creemos que debemos defender y fortalecer un comercio local y de proximidad que dé vida que dé alegría y que dé empleo de calidad

en que el papel del comercio no debe ser el de fomentar el consumismo o eventos diseñados para una finalidad consumista

para poner a disposición de la ciudadanía aquellos productos y servicios para la vida en su concepción amplia incluida por supuesto la perspectiva medioambiental y ecológica a la vez que esto nos preocupa la actividad económica del comercio nos preocupan también los impactos

y el comercio local como aquella redistribución entre el trabajo

de este comercio local reiteramos que no hay que oponerse por ello

porque son espacios que también generan empleo de forma importante quizá en proporción de una forma menor que el comercio local

tienen que existir de una manera controlada para satisfacer necesidades específicas de forma proporcionada y equilibrada

favorecen como ya hemos dicho muchas veces favorecen más

espacios comerciales y perjudican a los que no son tan grandes en definitiva

de los municipios y las ciudades vivas amables multifuncionales comercialmente justas socialmente equitativas culturalmente diversas y generadoras de empleo local

a los barrios vida y llena de gente y movimiento los espacios públicos y además dota a lo urbano de una personalidad propia pero va más allá

fortaleciendo circuitos de consumo de corto recorrido y mucho más ecológicos por todo ello las resoluciones encaminadas a reducir o a incidir en el impacto medioambiental de las grandes superficies como

el comercio local además desde diferentes asociaciones de comercio en euskadi han cuantificado el impacto que tuvo la crisis en el comercio local en la pérdida de cinco mil seiscientos establecimientos comerciales la mayoría de ellos pequeños

de los mismos fruto también de la crisis y de las propias reformas laborales

o el propio comercio electrónico también han influido negativamente en este comercio local de ahí a nuestras resoluciones concretas como parte de una solución más integral nosotras proponíamos la creación

que trate de corregir los impactos medioambientales y sociales que implican las mismas como una forma también de redistribuir recursos que el poder de mercado del que disponen las grandes superficies se vea compensado

que no arruine a los comercios locales por eso proponemos

concebido para que este tipo de comercios pague una cantidad extra por el impacto medioambiental y urbanístico que generan sea destinado íntegramente

mediante un plan de apoyo realizado con la participación por supuesto de las organizaciones representativas en el sector y como ya sabrán muchas de ustedes no estamos inventando nada este impuesto no es algo novedoso en la actualidad

en cataluña en canarias o en la rioja y seguramente también conocerán ustedes y creo que algún otro parlamentario lo ha mencionado

presentaron una batalla jurídica en contra de este impuesto sin embargo

avalaron su implementación en el caso del tribunal supremo en una sentencia firmada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho que afirmaba que la finalidad de desplazar sobre los establecimientos implantados como grandes superficies las incidencias negativas que generan sobre el medio ambiente

que su actividad genera constituye un objetivo constitucionalmente legítimo es decir que el impuesto que hoy aquí pedimos a través de las resoluciones que hemos presentado no vulnera el derecho a la libertad de empresa y además da respaldo a tres ideas fundamentales

concreta para apoyar el comercio local y creo que es eso lo que tratamos de hacer hoy elaborar medidas concretas que faciliten y defiendan y pongan el valor al comercio

además ya lo hemos explicado no existe impedimento legal para aplicarlo aunque nos empeñemos o se empeñen

y por último su recaudación que puede tener cierta relevancia alrededor de unos diez millónes de euros es completamente legal

que impulsen el comercio local y de proximidad y los empleos al mismo y es evidente que nos parecía importante y era parte de una de nuestras resoluciones más importantes en esa línea también hemos presentado resoluciones muy concretas con respecto

de la mañana nos parece fundamental y nos parece importante que haya un posicionamiento claro y que si de verdad no hay otros intereses y no hay más intereses detrás

no se permita que se siga dando cobertura a un proyecto cuyo impacto negativo se han cansado o se están cansado de reclamar diferentes colectivos diferentes plataformas

políticas además de estas hemos pedido el compromiso del gobierno para ayudar al pequeño comercio de proximidad

más eficiente y más sostenible y una de nuestras resoluciones en este sentido

con el objeto de que el pequeño comercio pueda responder tanto a los retos de la digitalización de la tienda física

como a la utilización de la tecnología para la venta electrónica de los productos del comercio local este plan además debe ser definido en medios y fines

duradero en el tiempo y contar con la estabilidad presupuestaria en esta línea además entendemos que partiendo de un acuerdo con las asociaciones

tanto para las asociaciones con sus webs redes sociales y plataformas de venta online como para los comercios de forma individual que contenga entre otros

la formación y el apoyo a las personas trabajadoras del pequeño comercio

la financiación de los costes priorizando la utilización del software no privativo la financiación a las asociaciones en todo lo referente a webs

y la financiación para posibles plataformas de transporte

tomando como referencia a las empresas vascas y que se aúnen con el doble objetivo de impulsar la economía local y de reducir los costes de transporte almacenamiento y distribución

para personas mayores o con dificultades de movilidad y la promoción de

a los productos y servicios que el pequeño comercio local proporciona porque una de las cuestiones que hemos reivindicado siempre desde nuestro grupo parlamentario es la cuestión que tiene que ver con la accesibilidad

además una cuestión en la que hay bastante trabajo que realizar en esta línea también hemos hablado de un plan

con respecto a las condiciones de trabajo de muchos de los empleados y empleadas y las trabajadoras del comercio como a los horarios

que se tenían que se realizaban o que se fomentaban hablábamos de reivindicar el derecho de estas personas trabajadoras del comercio al descanso y a la conciliación familiar y manifestábamos el rechazo a las aperturas comerciales en días festivos reclamando la derogación de la normativa estatal

a que en el ámbito de sus competencias no promovieran o si es posible evitaran esta práctica además instábamos al gobierno vasco a implicarse en la defensa

del sector comercial en las jornadas festivas y a considerar que la liberalización de los horarios comerciales perjudica al comercio local y de proximidad en beneficio

además hablábamos en una de nuestras resoluciones de la preocupación que nosotras teníamos en torno a la concentración de franquicias en ciertos centros centros urbanos o municipios de nuestra geografía y

pedíamos y lo que solicitamos es un estudio para baremar y medir y tener una fotografía bien clara de cara

las calles de los municipios los centros de las calles de nuestros municipios parecen las mismas y creemos que es una cuestión que es evidente que hay que estudiar

con respecto a las resoluciones del resto de grupos parlamentarios si bien estábamos de acuerdo con varias cuestiones

era el aumento del presupuesto porque todas las cuestiones que estamos hablando

si no hay recursos si uno no dota de financiación a todos estos planes y pequeñas medidas concretas que espero que sean muchas las que salgan a raíz de todas las resoluciones que hoy aprobemos y para eso como decíamos hay que aprobar o hay que aumentar el presupuesto y nos parecía interesante

esta propuesta además de toda esta cuestión todo el debate que hoy estamos tratando partía de que

quien ha ejercido de facto un papel fiscalizador en materia de urbanismo comercial

en materias en general del sector comercial siendo además por otro lado

asociacionismo fuerte los que acreditaban mayores ratios en los programas institucionales y definidos en la base colaborativa es decir que creemos que estamos en un buen momento y que este monográfico y escuchando al resto

es el momento para de verdad escuchar las voces de las y los representantes del asociacionismo comercial que llevan muchos años luchando

escuchadas y lo suficientemente representadas y participantes de toda la estructura

la parte institucional del sector comercial y en este sentido sí nos sentimos satisfechas porque creemos que sí que hay en los últimos meses un avance y un pequeño una pequeña apertura hacia las quejas y las reivindicaciones de este sector y creemos que hay que seguir trabajando en profundidad y con rigor

de inicio sobre el que trabajar además es evidente que estamos de acuerdo con todo lo que sea mejorar la gobernanza

de la comisión consultiva del comercio vasco nos parece una buena propuesta además entre las resoluciones presentadas también estaba por otros grupos también estaba el de la reactivación del pequeño comercio en las zonas rurales

nos parece importante y que creemos también que ha de ocupar un importante tiempo y un importante desarrollo

del departamento en definitiva creemos que es un monográfico del que van a salir propuestas concretas y además respaldadas por un consenso importante muchas de ellas que pueden ser muy positivas para el desarrollo

creemos además que con todas las diferencias existentes dentro de la cámara ha habido un esfuerzo que se viene trabajando en los últimos meses en este sector importante que esperemos que hoy se fructifique y

aprobadas en simples palabras sobre el papel queremos que de verdad se pongan en marcha las medidas que hoy acordemos queremos que se dote de recursos suficientes para poner en marcha

sean consensuadas contrastadas y compartidas con los representantes del sector con todos los representantes del sector

un tejido comercial en euskadi donde el

sea una parte fortalecida y donde realmente además lo hemos dicho muchas veces pero sea equiparable a lo que representa dentro

podemos decir que nos sentimos de alguna forma satisfechas agradecemos al resto de parlamentarias el trabajo realizado y esperemos que a partir de ahora

en base al trabajo de análisis de las propuestas de las entidades de comercio y contrastando con los programas los proyectos y las líneas de actuación del gobierno

propuestas de resolución comenzando con un llamamiento a la sociedad a las administraciones y a los diversos agentes del sector para articular medidas de impulso y conservación del comercio minorista y también del comercio de proximidad teniendo en cuenta la repercusión de esta actividad económica en el empleo en la economía vasca

hemos centrado las treinta y nueve propuestas en esos cuatro ejes de los que yo les comentaba esta mañana que para nosotros eran fundamentales la modernización

la competitividad del sector las herramientas que poníamos en marcha

esa mejora de la competitividad y la adaptación a los nuevos tiempos a los nuevos modos de comercio

desde hace ya unos días de intentar llegar a acuerdos con el resto de grupos en este caso de la oposición entendiendo que las propuestas de resolución que habían

refuerzos o mantenimiento de programas que se estaban llevando a cabo hemos conseguido llegar a algunos de esos acuerdos yo considero importantes

anteriores portavoces que me han precedido en el uso de la palabra de los elementos que para nosotros para los socialistas vascos

el pleno monográfico dedicado al sector del comercio en el día de hoy

y más clave todavía después de lo que se ha venido a realizar como pronunciamiento a primera hora de esta mañana

el gobierno vasco respecto a leyes que están vigentes

que son leyes de carácter básico también para la comunidad autónoma del país vasco y que por lo tanto hay que cumplir hay que velar también por su cumplimiento por mucho que algunos les guste más o les guste menos la aplicación de esas leyes en esta comunidad autónoma

que se propusiera o se hicieran propuestas de resolución tachando de carácter invasivo de las competencias autonómicas dichas leyes

pero lógicamente cuando esa invasión de competencias se pretende reformular a través de otras propuestas de carácter

a modo de resoluciones pero que pueden llegar a obligar al gobierno vasco y por lo tanto hacer que se incumplan las leyes no nos parece

y por tanto los socialistas vascos no hemos admitido ni vamos a admitir cuando llegue el momento de la votación cualquier propuesta de resolución por muy consensuada que esté que vaya a vulnerar lo que es el compendio legislativo ante el cual nos vemos no sometidos sino bueno estamos por velar por la del cumplimiento de las leyes

porque lo digo porque cuando se plantean en algunas propuestas de algún grupo parlamentario

que a nadie nos gustaba y que vienen de la legislatura pasada y curiosamente se propone por uno de los grupos parlamentarios que en aquel entonces en el año dos mil doce formaba parte del gobierno del partido popular en españa y que promulgó aquellas leyes hoy resulta cuanto menos chocante

esté en contra de la generación de las zonas de gran afluencia turística cuanto menos resulta chocante que se plantee que a través del desarrollo reglamentario se modifique la ley y digo que se modifique la ley porque generar lo que

del tejido asociativo pretende con esas zonas de gran afluencia turística no se puede llevar a cabo por desarrollo reglamentario tendríamos que modificar

al solitario estamos en una cámara parlamentaria en una cámara legislativa y creo que tenemos que ser todos los parlamentarios y parlamentarias suficientemente responsables como para determinar que algunas cuestiones no debieran incluso formularse se hablaba esta mañana de que el gobierno vasco estaba llevando una política débil y errática bueno

al gobierno yo sí quiero manifestar que de política errática nada este gobierno vasco está llevando su orientación política

está orientando su política en base a un programa de gobierno y está orientando su política en este caso específicamente destinada al comercio a través de un plan director de comercio del año dos mil diecisiete al dos mil veinte ese es el plan integral del comercio en euskadi ese es el plan que tendríamos que dedicarnos todos a ver si sus líneas de acción

ejes en los que se basa el plan director lo demás es hacerse trampas al solitario porque miren a mí me gustaría salir de aquí hoy pues efectivamente con un compromiso de que se cuadruplique el presupuesto del gobierno vasco en materia de comercio

ojalá tener más recursos no solamente económicos sino también medios humanos y medios materiales para que realmente se pudiera atender de la mejor manera posible al sector del comercio ante la coyuntura que está viviendo pero claro es que luego no vamos a encontrar

es que aquí han venido unos presupuestos unos presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi para el año dos mil diecinueve para un ejercicio en el que esas asociaciones parte de esas asociaciones que hoy nos acompañan y muchas gracias por haber venido parte de esas asociaciones estaban encantadas

encantadas yo estuve con ellos y a mí así me lo manifestaron podía haber una mejor o peor gestión y eso se podía haber limado pero estaban encantadas y qué ocurrió qué ocurrió que quienes hoy están diciendo que el presupuesto para el año dos mil diecinueve o dos mil veinte

fueron quienes realmente hicieron posible que nos encontremos ante una prórroga presupuestaria que supone volver al año dos mil dieciocho

esas esperanzas que ustedes habían tenido hay que reformularlas y encontrar los dineros necesarios para llevarlas a cabo así que no vale

y decir que estamos porque el presupuesto realmente sea solvente para sufragar los gastos las estructuras

cuando luego venimos aquí y planteamos el no votamos o no terminamos la negociación y entonces no hay presupuesto y entonces vamos a una prórroga presupuestaria

y claro que muchas veces ponemos por escrito maravillosas voluntades y luego a los pocos meses y aquí vamos a tener un ejemplo a los pocos meses resulta que oh cielos no hay presupuesto nos encontramos con una prórroga y este presupuesto para el año dos mil veinte

tenía y tiene más consignación solo espero que la negociación presupuestaria que se iniciaba creo que a partir de hoy según he entendido en los medios de comunicación llegue a buen puerto y realmente consejera pueda disponer

una de las resoluciones que se va a encontrar porque ha habido una mayoría que han consensuado que sea un presupuesto

y espero que de verdad sepan ustedes gestionarlo pero que luego también sean capaces de decir al tejido asociativo que si no se ha llegado a un acuerdo

hay corresponsabilidades y hay responsabilidades compartidas para que salgan adelante los presupuestos y si no no se juega si no no se juega con las expectativas del tejido asociativo

igual a alguien le hace mucha gracia pero a mí desde luego ninguna porque estamos con cosas muy serias y estamos jugando con las cosas del comer

se decía también que no había estrategia y que realmente el gobierno vasco había jugado a la confrontación pues nada más lejos de la realidad nada

por llegar a acuerdos con el sector por hacer realmente al conjunto del tejido asociativo al conjunto de los segmentos del tejido asociativo hacerles partícipes de todos y cada uno de los programas que estamos poniendo en marcha yo les decía cuando intentábamos consensuar alguna enmienda es que

es que tengo una relación que no sé si seré capaz de encontrarla pero oiga me puedo quedar y aburrirles a ustedes contándoles los nombres

se trata de autoexigencia porque estamos convencidos que esos programas

lógicamente habrá fallos yo no digo que no claro que es mejorable la coordinación claro que es mejorable la relación pero siempre y cuando haya una relación de sinceridad y que sea de doble vía de que el gobierno y la administración son sinceros

porque aquí lo que no vale tampoco es que se venga a contar a algunos unas milongas y luego resulta que a la administración se le cuenten otras porque claro

podemos tener discrepancias de fondo en algunos temas cómo no claro que tenemos discrepancias de fondo porque no opinamos igual porque no tenemos la misma ideología claro que no

de proximidad y el comercio minorista claro que nos van a encontrar

muchos muchos años cuando el gobierno tenía a socialistas en el gobierno cuando el gobierno no tenía socialistas en el gobierno

cuando ninguno de los que estaba aquí excepto el partido socialista firmaba acuerdos presupuestarios excepto el pp en alguna ocasión

con el gobierno y metía dinero para las asociaciones excepto esos momentos no ha habido por parte de los grupos políticos ninguna

basándose en las cuestiones del comercio no es verdad metieron ustedes

en el tema de lo que eran las cuestiones sociales pero no

basándose en el comercio ni media línea por mucho que nos

por supuesto que tenemos que velar por los derechos laborales cómo no por supuesto que tenemos que velar por la fiscalidad en el comercio qué es lo que hicimos los socialistas vascos y los nacionalistas vascos

el órgano de coordinación tributaria estudiara todo lo que tenga que ver con la fiscalidad en el comercio

eso es velar por la fiscalidad en el comercio y no venir ahora como salva patrias de no sé sabe qué historia a decidir que realmente hombre

pues no es verdad no es verdad y sí se ha hecho y se pretende hacer más

de esa historia del comercio online ya tuvimos ocasión de intervenir y de debatir pero hay muchas más cosas porque está también es verdad

el derecho de los trabajadores y eso de algo tendrá que valer también esos estudios que nos anunciaba la consejera esta mañana

el derecho de las personas consumidoras también está en juego

habituados y estamos cogiendo otros hábitos de consumo quién de esta cámara parlamentaria no ha tenido o no tiene a alguien que compre

y a través de esas plataformas que consideramos malditas

en plataformas como amazon hay alguien que no haya usado nunca amazon en esta cámara alguien pues enhorabuena

mesedez isiltasuna enhorabuena porque son ustedes mesedez porque son ustedes minoría

y lamentablemente sí sí como todos yo he sido la primera que ha hablado en

todos estamos cambiando nuestros hábitos de consumo la mayoría estamos cambiando nuestros hábitos de consumo ese es el gran problema

que tiene el tejido asociativo y el comercio sobre todo el sector del comercio más que el tejido asociativo y por eso hay que hacer verdaderos esfuerzos

no se nos puede llenar la boca de buenos propósitos cuando una cosa es predicar y otra es dar trigo

y hemos tenido algunos grupos parlamentarios de esta cámara responsabilidades en la gestión pública no se puede venir haciendo planteamientos de que ahora es cuando debe de ponerse en marcha programas en favor del comercio

responsabilidades en la gestión pública y a mí ya me gustaría saber cuáles eran los planes integrales del comercio al menos en mi territorio histórico con eso me conformaría y yo creo que tampoco podemos ser

me alegro de que hayan ustedes despertado porque estaban un poquito así como dormidos

y lo digo porque yo soy de las que pienso

si algo positivo ha tenido y tiene el debate

en el debate sobre el sector del comercio a mí me queda una pequeña frustración una pequeña frustración yo estoy convencida de que sí detrás de estas paredes

más sosegada y con más calma hubiesemos podido participar de programas y de conocimientos sobre todo lo que se estaba haciendo porque yo me quedo con la duda de si realmente lo de hoy tienen que ver con una verdadera voluntad de que el comercio avance

planteamientos políticos exclusivamente para

el adversario político queda mal delante del tejido asociativo o del sector comercial y lo digo porque bastante desconocimiento en la cámara respecto a determinados programas y cuáles son las consecuencias que pueden tener y creo que cuando uno toma

de ser parlamentario parlamentaria vasca tomamos una serie de decisiones en unas resoluciones debiéramos de saber también cuáles son las consecuencias

tienen un consenso unánime no todas lamentablemente no todas y porque desconocemos también cuáles serán las consecuencias de muchas de ellas

ojala todas positivas pero me temo por algunos en fin algunas proyecciones que una puede hacer de por dónde van las cosas y las orientaciones en materia de comercio que eso no va a ser así

expectativas buenas yo espero que realmente se sientan ustedes amparados por todas y cada una de las resoluciones

porque tendrán un consenso mayoritario pero espero de verdad que no nos tengamos que arrepentir

de alguna manera porque no llegan a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto y yo les hablaría de algo que a mí sí me deja un run run

y es la cuestión del cambio de estructuras que se propone con la inclusión de la hostelería y del sector de los servicios

y sobre todo en las ayudas mec porque yo creo que

pero creo que nos estamos equivocando porque la hostelería hoy en día es verdad que tiene retos pero no son los retos que tiene el comercio

a los que se está enfrentando el comercio en euskadi esos no son los cambios que tiene la hostelería y cuando hablamos de programas de modernización

estamos hablando de una modernización que suponga inversión fuerte para modernizar para realmente adaptar el comercio a los nuevos tiempos y me temo que el hecho de ese cambio en la estructura para conseguir mayores cantidades

no va a ser la finalidad con la que está pensado ese plan de modernización y

sí hoy cualquiera nos hacemos abstracción en el sitio en el que estamos y pensamos los problemas de la hostelería seguro que nos damos cuenta de que no son los problemas que tiene el comercio minorista en euskadi por lo tanto creo que esa propuesta

a contrapié en fin yo creo que lo importante hoy

al menos seamos todos partícipes de un gran cambio y al menos una reactivación de un asunto como es la comisión consultiva de comercio creo

a ese consenso ese va a ser un foro que creo que es importante le viene bien al gobierno

y espero que felizmente podamos ver enseguida esos cambios en la comisión consultiva y también algo que a mí me parece que es

del comercio tradicional del comercio histórico si hemos conseguido darle relevancia a ese tema por lo que supone también de regeneración de rejuvenecimiento generacional y de trasmisión del comercio entre generaciones

todos los esfuerzos y todas las bonificaciones nada más y gracias eskerrik asko

ere arratsalde on me dirijo en primer lugar a ustedes a todos los que nos acompañan esta tarde

tampoco me hace una especial ilusión porque creo que en lugar de debatir sobre temas concretos sobre problemas concretos al entrar en todo

y con dos horas para decidirlo todo y con cuestiones cruzadas entre los diferentes grupos

saldrán un montón de resoluciones que lo único que van a crear es mucha frustración y sobre a todo a ustedes pues dirán para qué se junta estos señores estas señoras para decidir cosas que luego son por ejemplo

bien porque tenemos leyes que nos limitan bien porque son materialmente imposibles etcétera etcétera etcétera entonces vaya esa verdad o mi verdad en este caso por delante y yo

cuáles son los objetivos generales de mi grupo de mi partido en lo que tiene que ver

con el comercio con este sector las propuestas que hemos presentado junto al grupo socialista vasco tienen que ver en su gran mayoría con todos estos temas a los que me he referido

compartimos todos los grupos de la cámara luego la política

supone el gestionar las contradicciones de

o dejamos de gobernar verdad porque parece que cuando venimos a esta cámara lo tenemos todo muy claro después cuando estamos en ciertos ayuntamientos

a todos no crean no crean que yo me quito nuestros sambenitos de encima tampoco

sector pero no olvidemos no olvidemos que en cualquier caso el objetivo siempre es el de acertar con los deseos y necesidades del consumidor actual

sino el hombre para el sábado es decir no podemos por mucho que lo intentemos por mucho que queramos penalizar a algunos obligar a otros

en esta cuestión por eso debemos trabajar conjuntamente tanto las instituciones públicas como el sector por eso nuestras propuestas de resolución van encaminadas a ese trabajo en común

instituciones y común también obviamente como vengo diciendo con el sector con todo el sector con todo el sector porque

o tenemos cierta tendencia a confundir una parte con el todo

una parte del sector con todo el sector y si caemos en estos juegos

un flaco favor al mismo porque decía yo esta mañana y lo vengo manteniendo el mayor enemigo del comercio de proximidad

otro tipo de comercio con el que probablemente llevan ya probablemente no seguro llevan conviviendo cincuenta años que el reto del sector no es entrar en guerras sino como digo acertar desde el carácter desde ese al que me refería esta mañana y el saber hacer

en definitiva impulsar la búsqueda de alternativas para revitalizar nuestras zonas comerciales urbanas y rurales alternativas para reconocer a las mujeres ese trabajo silencioso

para enfrentarse a los retos que tienen por delante no podemos olvidar que a día de hoy el comercio es un sector en el que se requiere una alta cualificación esto ya no tiene nada que ver no es lo que era antes de la aldea global también requiere

importante más costes que una empresa de servicios un local un almacén un producto el riesgo es mayor y si se suma que es un sector sobredimensionado y que está viviendo una revolución en la forma de conectar con los clientes el emprendedor tiene que estar muy preparado y formado en muchos aspectos de la gestión para lograr el éxito de su proyecto

permítanme que me repita lo he dicho esta mañana pero es que creo que conviene recordarlo a las administraciones públicas a los responsables políticos

gestionar de forma eficiente los espacios urbanos e incentivar de manera inteligente las sinergias entre el comercio el turismo la hostelería o incluso por qué no la cultura

profundizar en él emprender innovar y ser consciente del momento en el que vive siempre como digo centrado en el cliente

unas breves palabras permítanme que cambie momentáneamente de tema respecto al proyecto de zaldunborda que ya se ha mencionado en algún caso seré breve porque

en comisión mire señor casanova nosotros creemos y respetamos el principio de legalidad y la distribución de competencias en instituciones

parece que usted no por lo que viene diciendo últimamente

tiempo tendremos para seguir hablando más en profundidad de este tema como digo pero sí quiero dejarlo claro

al ayuntamiento de hondarribia a mí personalmente a mí me parece bastante más normal que un proyecto esté de acuerdo con él o no de más de dos años

continúe con su marcha que un parlamento que ahora en su persona se siente atacado ultrajado ninguneado pueda elaborar una ley en quince días me parece bastante más normal

cuando toque decía usted la semana pasada que esto lo arreglaba el lehendakari con una llamada ya hablaremos de esto también

le gusta el cine ha visto la película de la selva esmeralda

si dijera a las personas libres qué tienen que hacer dejaría de ser el jefe casualmente lo que usted nos planteaba

bien yo sé que los y las comerciantes son conscientes de su situación y que hacen oídos sordos a los cantos de sirena yo sé

pero desde las administraciones públicas debemos acompañarles en este empeño en constante colaboración y comunicación

quizás haya llegado el momento de dar menos discursos de hacerles más caso y de comunicarnos más con ellos y con sus necesidades por eso
estos doce minutos se los dejo a la señora presidenta eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna erantzuteko txandan casanova jaunak eh bilduren ordezkariak dauka hitza

para regular aquellos temas que sean competencia y que entren dentro del ámbito de lo municipal de la misma forma que un ayuntamiento no puede decidir poner una central nuclear o puede saltarse otro tipo de normas tampoco una medida que tiene un impacto extramunicipal

y como no solo yo sino toda la cámara piensa eso porque ha aprobado una ley que dice eso tenemos el derecho y la obligación de oponernos al proyecto de zaldunborda porque es una extralimitación de competencias

se van cayendo yo creo que ha resultado muy aclaradora su intervención porque demuestra que efectivamente en irún

por parte de su partido queda muy bien porque todo el comercio de irún va a ser laminado si eso sale adelante pero aquí es otra cuestión ustedes

y defender directamente este proyecto están diciendo una cosa en el ayuntamiento de irún que no se atreven a decir aquí porque quizás en realidad lo que ustedes están

no les gusta el pleno monográfico yo creo que a ustedes lo que no les gusta es perder votaciones

lo que no le gusta es perder votaciones lo que no les gusta es perder votaciones y habla de frustración habla de cosas imposibles podemos suspender también los plenos ordinarios porque básicamente las pnl tienen la misma entidad que las cuestiones que vamos a aprobar aquí

pues dejamos de hacer el parlamentarismo y que funcione el gobierno solo

y la señora corcuera bueno yo creo que si este pleno ha sido hasta ahora un pleno

porque hemos detectado por parte del gobierno un cambio de actitud

hemos detectado que se ha incrementado el diálogo con los grupos políticos y también con el sector de la asociacionismo y por eso no hemos venido aquí a hacer ajustes de cuentas ni pasar facturas ni a escenificar cuestiones ajenas al mundo del comercio usted sabe que el mundo del comercio en relación al comercio

en la cual la oposición forma una mayoría porque ha coincidido

podíamos haber aprobado lo que quisiéramos podíamos haberle dejado al margen de todo el debate y no lo hemos hecho como tampoco lo hicimos en la ley de grandes establecimientos comerciales porque aquí no hay intereses oscuros

coincidencia o no coincidencia por las posiciones del gobierno por parte de la oposición pero no hay un interés

bastante graves que las asociaciones no dicen una cosa en un sitio y otro igual si cierta parte de las asociaciones tienen miedo a decir cosas en público o tienen miedo a decir cosas delante del gobierno es porque conocen la forma clientelar de funcionar de algunos sectores de la administración

reflexionen ustedes sobre esa cuestión y me dice que no ha habido una política errática le decía anteriormente que he procurado no ser demasiado beligerante con el gobierno en mis primeras intervenciones porque precisamente ahora es cuando estoy notando un cambio de actitud que no ha habido una política errática

la pasada legislatura ya propusimos aquí que el plan territorial sectorial

se modificara para cerrar el boquete legislativo que nos había dejado la sentencia del supremo y el psoe votó en contra

porque no es nuestra intención excluirles sino defender legítimamente los planteamientos que nosotros hacemos

de que se está formando algo parecido al nuevo ikusmer y que además lo están haciendo las cámaras en los pasillos

de muchas de las decisiones trascendentales que toma este gobierno porque no tiene la deferencia de tener un canal sistemático de información y hablo de ikusmer como podría hablar de otras muchas cuestiones ustedes no tienen un director de comercio a tiempo completo ustedes

esa importantísima responsabilidad que debería ocuparle veinticuatro horas al día con ser el portavoz del partido socialista en el ayuntamiento de santurtzi

ustedes se han pasado con toda la consejería haciendo campaña porque uno era candidato en baracaldo otro era candidato en santurtzi otra era candidata en gasteiz han tenido toda la consejería

ez dituzte izan behar zilegiak ez diren abantailak ezin dugu onartu que el hombre más rico del mundo que es el dueño de amazon

por evitarlo sabemos quiénes están detrás del pequeño comercio vasco son estas personas que están aquí y otras muchas como ellas sabe quién está detrás de las grandes superficies quiénes son los dueños de las grandes superficies en el país vasco de garbera unibail rodamco empresa francesa del boulevard ing aseguradora holandesa

socini de madrid del max centre el fondo sierra portugués

lar españa real estate socini madrildarra de usurbil

queremos poner un impuesto un impuesto que podía poner diez millónes en el bolsillo del gobierno vasco

entre otras cosas para el apoyo al sector del comercio y sí es posible hacer un acuerdo

para que legislatura tras legislatura y gobierne quien gobierne eso se llama un acuerdo de país y eso se ha hecho a iniciativa del partido socialista se hizo

hoy esta cámara lo va a hacer veremos si tienen la dignidad de responder a este sector y de materializarlo eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna lópez de ocariz andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea no tenía intención la verdad de salir otra vez a

me tiene confundida en general porque la verdad es que una cosa es lo que pasa detrás

y detrás de esta cámara cuando se llega a acuerdos se consensua se dialoga y otra es cuando usted aparece aquí con su intervención y parece que no hay acuerdos que no hay consensos y la verdad que me sorprende y ha habido un momento que he pensado vamos a ver más que nada lo digo para el resto de parlamentarias cuando votemos vamos a visibilizar que hay muchísimas resoluciones con acuerdos y con consenso pero es que si uno le escucha a usted parece usted a veces de la oposición se está quejando

y hágalo pero creo que es una actitud completamente diferente al menos a mí me tiene confundida además de su autocomplacencia es que de verdad

y entiendo que sale aquí y nos recuerda todo lo que hace el gobierno

nos las lee nos las vende pero claro es que a la mañana es una

entonces si la situación del sector es una situación preocupante y evidentemente hay unos programas unas líneas de trabajo

hay que mejorarlas hay que actualizarlas hay que desarrollarlas y parece que contar con todo el mundo para hacerlo es que es simple

pues si ya hay usted ha transado cosas si ya hay

y detrás no lo comprendo muy bien pero bueno como también me pasó esto

y creo que ha sido no me acuerdo bien ahora si ha sido el señor grajales o usted no creo que ha sido el señor grajales ahora pensándolo bien ha sido el señor grajales el que ha dicho las cosas que me han hecho levantarme más del asiento

el que ha hablado y de verdad de que estamos creando frustración estamos creando frustración por qué porque no se van a cumplir las resoluciones señor grajales

cuando realmente la noche antes de aprobar al día siguiente esta ley

y se da apertura a un proyecto como el zaldunborda explíquemelo usted porque creo

está clarísimo y se lo agradezco eh se lo agradezco porque ya son horas y yo prefiero la honestidad siempre

yo de verdad soy una persona súper comedida en esta cámara súper comedida pero claro sabe

me alegro me alegro en realidad porque si no fuera tan comedida

y resulta que si no es por el movimiento de los grupos de la oposición no

y había una inacción y había una falta de regulación durante años

es verdad que usted no estaba al principio igual fue eso y yo he pensado igual fue eso igual como él estuvo quince días solo vio esos quince días igual fue eso señor grajales y entonces no hay nada absolutamente de lo que hablar pero es que usted estuviera como bien sabe porque sé que lo sabe ya había un trabajo previo

importante y creo que se sacó una ley importante en la que se limitaba

que justo una noche antes se apruebe un proyecto así

consecuencias negativas tanto a los comerciantes como al entorno

es que de verdad no quería salir pero nosotras la verdad que estamos contentas y lo volvemos a repetir y es verdad estamos contentas con la nueva forma de hacer del gobierno desde el departamento desde hace unos meses al menos

pero creemos que hay un cambio de actitud importante y siempre hemos hablado en esa línea nos iban a encontrar y entendemos que las resoluciones que hoy sacamos adelante para que las políticas del gobierno vasco en esta materia se desarrollen

no se impongan no se confronten con el tejido asociativo porque claro

todo lo hacemos bien todo lo escuchamos solo que aquí cuentan una cosa y en el otro lado cuentan otra

no lo que hay que hacer de verdad y creo que este es yo

pues mire pues no hacemos aquí absolutamente nada porque total

mejor no hacemos nada pero creo todavía que tiene sentido entonces vamos a hacer que las resoluciones que hoy aprobemos

creo que son muy positivas y con las que me voy muy satisfecha se pongan en marcha y de verdad las cumplamos eskerrik asko

no es que me ha dejado un poco preocupada cuando decía no es que parece usted de la oposición pues hombre

una es más vehemente a la hora de expresarse oiga mire es que desde por la mañana yo que he estado muy atenta a todas las intervenciones para discursos catastrofistas y alarmistas hemos tenido unos cuantos

datos de cómo estaba la situación del comercio cómo lo veíamos y he dicho algo muy importante señora garcía

al menos la consejera desde luego no se vanagloria de ninguna autocomplacencia ni siquiera su intervención ha ido en ese sentido para nada

en la autoexigencia pero como las políticas se evalúan creemos que las evaluaciones que se hacen y lo demuestran los indicadores no se va por mal camino

pero no se va por mal camino y se está acertando en las líneas y en las políticas orientadas a la competitividad del sector del comercio en euskadi y yo creo que eso es muy importante a tener en cuenta porque sí de algo me quedo con lo que hemos tenido en el día de hoy es que efectivamente hemos llegado a acordar y no podía ser de otra manera cuando decía el señor casanova es que os podíamos haber marginado

alguna satisfacción personal yo creo que no nos conocemos y creo que no es ese

yo lo que sí creo es que hemos venido aquí al menos el partido socialista

lo que hacemos sabemos dónde se puede mejorar donde están los errores porque siempre hay errores porque somos humanos claro que podemos

pero tampoco por el hecho de que alguien proponga unas determinadas cuestiones tiene la razón divina porque no la tiene cuando no hay una uniformidad

no podemos venir aquí como si fuera palabra de dios lo que cada una de las asociaciones está planteando creo que somos adultos para oírles

yo creo que no he mordido a nadie no creo que haya echado a nadie al contrario creo que

porque son los primeros afectados y porque seguro que tienen soluciones pero también siempre les he dicho yo conozco cual es

y cómo se vive desde una institución la visión global de cómo tiene que funcionar un municipio igual el tejido asociativo del sector del comercio lo ve de una manera muy específica un ayuntamiento está viendo por donde va la actividad económica de todo el municipio y tiene que tener en cuenta al sector del comercio pero también al sector del turismo claro y también al sector industrial de ese municipio

y a las asociaciones porque nos han facilitado las propuestas con antelación para que las pudiesemos analizar algunas de esas propuestas marginaban al municipio porque lo consideran un enemigo un adversario y no hay nada más

hay que trabajar en colaboración y en coordinación no hay que marginar al municipio pensando

es que no va de eso la colaboración interinstitucional y a mí me parece muy importante el compromiso del gobierno para mediar

ante competencias que no podemos ejercer y que están haciendo que el comercio vasco este viviendo mal esta situación por eso es importante de que el compromiso de la consejera por eso es importante ese foro porque está hecho en positivo y al menos el partido socialista en todos los acuerdos que hemos transado con bildu con podemos

una oportunidad en esas resoluciones porque hemos intentado hacer pedagogía no porque resulte más populista o más demagógico el hecho de decir señores y señoras el tejido asociativo les compramos todo no

de las propuestas que hace el tejido asociativo y se lo hemos hecho saber en las ocasiones en las que desde luego han estado conmigo

y saben cuál es conocen también la opinión de la consejera claro que se ha reunido más de cuarenta veces me comentaban que habían tenido reuniones

y han tenido más de cuarenta reuniones están muy puestos igual hay que mejorar esa relación claro que sí como no ahí estamos dispuestos que nadie entienda que en el gobierno tiene un adversario o que el gobierno está luchando por no sé qué intereses ocultos y una última consideración respecto a la dirección de comercio mire cuando un director de comercio en este caso está bajo la ley de incompatibilidades y se está cumpliendo la ley de incompatibilidades

además perfectamente sin desatender ninguna de sus funciones como director de comercio cualquier otra opción de servicio público como en este caso formar parte

de una corporación municipal no hay ni medio reproche que hacer

no es bildu quien para decir que alguien que tiene

sea municipal o sea foral no pueda dedicarse a otra cuestión porque ustedes son los primeros tienden mucho a acusar a poner el dedito y luego resulta

cuando yo digo lo que hacemos entre todos

señora garcía y le voy a dar la razón en que algunas no muchas de las cuestiones que hoy aquí se han planteado y muchas de las propuestas de resolución

le he pillado y es que ustedes no van a cumplir con lo que hoy se diga aquí caramba pues con lo que es ilegal y que ustedes plantean no no

no vamos a cumplir con lo que no sea coherente con lo que el gobierno vasco tiene encomendado no vamos a cumplir en materializar

cuestiones que no tienen que ver con el departamento de comercio consumo y turismo

claro el gobierno tendrá que llevar adelante aquello que le corresponde no lo que ustedes le están pidiendo que haga de otra manera y dicen no y de esta manera

pues claro no señor casanova claro no una cosa es el debate político otra cosa es

y otra es venir aquí a decir soy el más amigo de todos los que vienen aquí

que son imposibles de cumplir y eso también es honestidad en política honestidad decirle a la gente la verdad no coger letra por letra lo que le dicen que ponga ponerlo sabiendo que es imposible a partir de ahí

está muy bien a mí lo que me molesta es que ustedes utilicen a esta gente se junten la izquierda independentista la izquierda vasca la izquierda liberal conservadora

lleguen a acuerdos para pegarle a este gobierno utilizando a quien no hay que utilizar a quien hay que caminar junto

escuchar y a quien en última instancia hay que decirle la verdad lo que se puede y lo que no se puede conseguir en esta vida eso

hombre a vanagloriarse no pero se podrá venir aquí podrá venir la señora consejera a decir lo que hace podrá venir a decir yo hago esto y esto y esto a pues si nos ponemos así claro ustedes también pueden venir aquí

muchas de sus propuestas de resolución precisamente decían hagan esto

pero bueno en fin me ha dado la sensación de mucha retórica y poco conocimiento del medio el ayuntamiento de hondarribi que lleva dos años trabajando en un proyecto

ya veremos si el proyecto es bueno o no de momento ellos piensan que es bueno

en este país también parece que lo que es bueno para irún o lo que es bueno para oiartzun es malo para hondarribi yo todavía no lo sé por qué pero bueno ya entraremos al detalle

el ayuntamiento de hondarribi ha intentado

pasa por encima una ley que efectivamente señora garcía

ya sé que también yo llegué tarde pero también como he dicho aquí sigo afirmando es una ley que se hizo corriendo y de prisa en quince días otra cosa es que todos estemos de acuerdo

y supongo que es ley desde el principio hasta el final que no será solo ley

y no seré yo quien les dé la pista pero si creen que hay algún ayuntamiento por ahí que se está saltando alguna ley quizás no haya que venir a protestar aquí ir a algún otro sitio

no seré yo el que les dé las pistas en estos debates me suelo acordar yo aquello que decía

decía pobre de aquel que nunca se equivoca porque nunca tiene razón